elkarrekin podemos trae de nuevo a esta cámara una iniciativa para dar un impulso mayor a las políticas de igualdad y contra las violencias machistas

en esta ocasión nos ocupamos del ámbito del deporte en nuestro programa nos comprometimos a mejorar la legislación autonómica vigente en la materia pensamos

va a contribuir sin duda a mejorar lo para las mujeres y los hombres para la sociedad en su conjunto en definitiva en los dos últimos meses

relacionadas con la violencia simbólica y el deporte en los municipios de bilbao o vitoria gasteiz se han aprobado propuestas presentadas por nuestras compañeras de udalberri y podemos vitoria gasteiz para eliminar la figura de la mujer como meros objetos sexuales

o publicidad de eventos deportivos con la aprobación por unanimidad de esta iniciativa hoy impulsamos coherencia de las políticas en los diferentes niveles de gobierno y consolidamos

para prevenir y erradicar la discriminación desigualdad y violencia contra las mujeres es un paso más sin embargo queda mucho por hacer y desde una visión más global del problema es necesario impulsar otras medidas más amplias como las que hoy vamos a aprobar esta transacción dicen las expertas

en los niveles profesionales es donde mejor se visualiza este problema tenemos diferentes informes y datos que así nos lo confirman los medios de comunicación

se hacían eco de las denominadas clausulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales requisito que se introduce entre los supuestos que provocan una resolución

la práctica de deportes de riesgo o la conducta

también el trabajo de los medios son reflejo del lugar que se da a las mujeres en el deporte y al mismo tiempo como generadores de opinión son responsables de la difusión y proyección

y proyección que se las da de hecho no tienen más que encender la televisión y en concreto poner la etb para ser conscientes de ello y comprobarlo

y periódicos de información deportiva realizado las temporadas dos mil quince y dos mil dieciséis en ese periódico se publicaron

solo mil diecisiete es decir el seis coma cuatro por ciento informaban en exclusiva de mujeres cuando las noticias

menos del diez por ciento de las informaciones deportivas publicadas destacan el deporte femenino en la cabecera de la información generalmente las mujeres

en términos cualitativos en lo que tiene ver con el contenido y enfoque de las escasa noticias que se encuentran hay un número relevante que llama la atención de cualquiera

o se centran en aspectos personales privados de las deportistas

rasgos o características físicas o vestimenta no deportiva de las mismas nos encontramos a menudo con noticias que intentan destacar a través precisamente de su vestimenta

aspecto físico que las mujeres deportistas profesionales que pueden ser también femeninas entendida la feminidad desde una concepción patriarcal cuando las mujeres son protagonistas de la competición el tratamiento en los medios en la mayoría de los casos es claramente machista

los protagonistas de eventos y competiciones deportivas las mujeres son omitidas o aparecen con frecuencia

de objetos es habitual utilizar a las mujeres de forma reiterada como reclamo publicitario y de consumo y generando con ello la perpetuación de los roles de género

en general se trata de mujeres que las empresas organizadoras

eventos deportivos colocan en lugares visibles para promocionar sus productos o captar la atención del público

esté totalmente desvinculada de la actividad deportiva y del producto en cuestión así aparecen mujeres jóvenes de belleza estereotipada en líneas de salida meta

antes durante y después del evento hay formas sutiles más discretas que reproducen y atornillan a las mujeres en

los polideportivos no son espacios libres de acoso y violencias para las mujeres

también podemos encontrar expresiones de micromachismo en la que se cosifica a las mujeres sin ir más lejos en un estadio de fútbol de primera división de euskadi durante los descansos

un anuncio publicitario invitaba evidentemente a los hombres

en una buena compañía en un establecimiento hostelero

no tenían que ir acompañados de mujeres porque en ese local se encontraban

en el ámbito deportivo podemos hablar también de la diferencia salarial la desigualdad de oportunidades para entrar y mantenerse en la alta competición es tan fácil como

en el athletic de bilbao y lo que ganan las mujeres que ganan tan poco que tienen que buscarse otros trabajos

a la práctica de ciertos deportes fuertemente asociados en nuestra sociedad

la falta de apoyo material pero también el desigual apoyo para las competiciones y equipos de niñas y niñas en el nivel escolar

árbitras y cuando lo consiguen su desempeño es desacreditado por su condición de mujeres hace unos días tuvimos conocimiento de un episodio de violencia

segunda regional de la liga de fútbol cito textualmente mujer tendrías que ser eres una hija de puta ponte contra la pared que te reviento y te mato me cago en dios con la tía de los cojones por qué nos traen mujeres este

hay que reconocer al árbitro del encuentro que supo identificar y reflejar en el acta que su asistencia había sido objeto de violencia machista

cero complicidad los obstáculos también persisten son difícilmente salvables para llegar a los puestos de decisión en juntas directivas o para entrenar equipos masculinos

los directivos nos consta que la unión de federaciones deportivas vascas está haciendo esfuerzos por revertir esta situación

en su página web se puede encontrar una pestaña denominada igualdad de género con una guía para incorporar la perspectiva de género en las federaciones deportivas y tienen un plan de igualdad

sirva para fortalecer y dar un nuevo impulso a estas acciones iniciales como ya se ha mencionado en infinidad de ocasiones en esta casa la desigualdad y discriminación son el caldo de cultivo para que sucedan el abuso y el acoso en tiempos donde está muy presente hablar de la violencia que rodea los espectáculos masivos de fútbol y que se produce dentro de los mismos es necesario señalar y subrayar que esta violencia tiene componentes machistas que no pueden ser analizados y tratados como un aspecto de violencia en el deporte en la guía para prevención del acoso y el abuso sexual a mujeres en el deporte publicada por emakunde en dos mil quince se afirma cualquier intento de estudio análisis acerca de la violencia contra las mujeres en el ámbito deportivo quedaría invalidado si se partiera de considerarlo un aspecto de la violencia en el deporte sería

además investigaciones llevadas a cabo en canadá estados unidos dinamarca reino unido república checa francia grecia y noruega

por ejemplo un estudio realizado en noruega en dos mil cuatro reveló que un veintiocho por ciento de las deportistas de élite había sufrido acoso y o abuso sexual

había sido víctima de acoso sexual las investigaciones consultadas coinciden en que no hay diferencias significativas en la existencia y prevalencia del acoso y el abuso sexual

deportiva llevada a cabo de forma individual o colectiva sin embargo se han encontrado un mayor índice de acoso

a principio de dos mil catorce se han publicado resultados de una investigación llevada a cabo en tres universidades de cataluña

estudiantes de ciencias de la actividad física y el deporte los datos revelan que estas mujeres perciben acoso sexual por parte de los entrenadores a través de los siguientes comportamientos contacto físico comentarios despectivos sobre las mujeres comentarios acerca de la apariencia física propuesta de relaciones sexuales miradas inaceptables etcétera

no existen datos cuantitativos acerca de la existencia y prevalencia del acoso y el abuso sexual a mujeres en el deporte sin embargo según las declaraciones de mujeres deportistas y exdeportistas así como mujeres profesionales del ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte

entrevistadas para elaborar la guía que estamos citando en la comunidad autónoma vasca sí existe

había sido mi profesor de natación cuando tenía diecisiete años

él era director de un importante club deportivo y fui a pedirle trabajo

agarrando mis pechos con sus manos mientras me decía siempre me has gustado mantuve la calma mientras eras menor de edad y le dije

esto está ocurriendo en euskadi también recoge testimonios de acciones naturalizadas y ampliamente extendidas en las que mujeres dicen tendríamos unos quince años el entrenador nos pegaba un cachete en el culo cuando íbamos a salir a jugar al campo esta realidad

con este acuerdo transformamos la indignación en propuestas concretas en medidas y políticas que terminen con estas prácticas que vulneran de forma reiterada los derechos de las mujeres a través del primer punto con la instalación del grupo de trabajo específico bajo la órbita de la comisión

se pretende aunar los esfuerzos y acciones puntuales que se vienen realizando

que en el corto plazo sea herramienta de orientación y referencia para todos los agentes que gestionan instalaciones públicas organizan y patrocinan eventos y competiciones deportivas

la cuatro barra dos mil cinco para la igualdad de mujeres y hombres debemos usar los mecanismos existentes sin duda

en cuarto lugar promovemos más visibilidad de las mujeres en el deporte más en la televisión más mujeres y mejor valoradas en la sociedad

a través del proyecto de ley que se formulará en esta legislatura

esperamos contribuir a una mayor igualdad en el mundo deportivo así como a prevenir y a erradicar las violencias machistas que se producen en el mismo eskerrik asko

lehendakari señoras y señores parlamentarios con brevedad porque la señora arana ya ha enmarcado

de la proposición no de ley y la enmienda de transacción pues intervendré para decir que estamos de acuerdo con la enmienda de transacción que se ha ofrecido a la aprobación de esta cámara

en relación con el tema pues con una enmienda de totalidad que buscaba desde luego no podría ser otra cosa que incidir en el acuerdo

emakunde al instituto vasco de la mujer en el liderazgo de este tipo de actuaciones

dependiente del gobierno vasco y de lehendakaritza y yo creo que además esas son sus funciones pero bueno en cualquier caso

proposición no de ley original no venía nada de eso pero bueno era bueno buscar un concierto entre las instituciones

de ese texto y quienes pueden participar en ello efectivamente el deporte para nosotros y para todos qué es sobre todo es correa de transmisión de valores de convivencia

desde luego de respeto de igualdad de actitudes positivas en la vida y lógicamente la eliminación de cualquier

es cierto que en esta cuestión también se ha trabajado se sigue trabajando hay mucho por lo que avanzar la propia

mete este tipo de objetivos y al deporte en concreto con nombres y apellidos en lo que es el trabajo por

desarrollo sostenible en lo ciudadano en lo cívico en lo convivencial dentro de la declaración de la agenda dos mil treinta para el desarrollo sostenible

ya habla del deporte como también facilitador importante del desarrollo sostenible

y los jefes de gobierno que apoyan esa agenda dos mil treinta reconocen

en cuanto a la promoción de la tolerancia y del respeto

la educación y la inclusión social está bien claro que aquí entra en valor también de una manera por las organizaciones internacionales el deporte como elemento de inclusión como elemento de no discriminación como

y de respeto y eso es por lo que tenemos que trabajar efectivamente también

eso lo ha dicho también declaraciones la propia organización

está ahí o sea la enmienda de transacción que desde luego vamos a votar a favor

de grupos de trabajo específicos con organizaciones no solamente con entes institucionales

que identifique esas medidas de adecuación frente a la violencia machista frente a la discriminación en el deporte

que se haga cuanto antes y para que se pongan en marcha también cuanto antes y que los pongan pues

y las instituciones que lo lleven adelante y las propias federaciones y los clubs deportivos todo el entramado deportivo

desde luego ese punto también de implementar acciones con el objetivo de eliminar la violencia machista de los eventos deportivos pues bueno tiene que ser apoyado hay que identificarlos desde luego pues cuando es así

que trabajar en ese sentido por la igualdad por la ausencia de esas actitudes discriminatorias machistas o violentas y ahí estamos todos implicados

en todos los ámbitos y en este caso en el deporte muchos estamentos desde los propios deportistas

los clubes los espectadores los jueces

con control efectivo de la aplicación de la ley cuatro barra dos mil cinco pues como la señora arana ha dicho pues

el impulso en cualquier caso estas cosas no se hacen si no hay trasmisión si no se involucran los medios de comunicación que a veces pues también

incorrectos en relación con identificar situaciones que no son de igualdad por eso mismo toda la sociedad tiene que avanzar y tiene que

campañas de sensibilización sobre la participación de mujeres y hombres en el ámbito del deporte en condiciones de igualdad y no discriminación pues bueno es un elemento fundamental y lógico y desde luego tiene que ser apoyado

incorporar criterios específicos contra la violencia sexista en el ámbito cultural dentro de lo que se puede considerar las fiestas deportivas los eventos deportivos

necesario y que en relación con los informes que se harán

actitudes sexistas machistas no se vuelvan a producir

identificadas y neutralizadas en el deporte muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias señora presidenta después de las personas que han intervenido pocos datos más voy a dar y voy a relatar más la iniciativa que se ha consensuado porque efectivamente

no solo estamos de acuerdo es que la hemos compartido desde la primera

comparto y aplaudo además los motivos que han llevado a presentar esta propuesta que se refiere a la violencia machista en los eventos deportivos en concreto lo diré como lo décimos siempre en cuanto a la violencia contra las mujeres es la expresión más grave de otra cosa que la fundamenta y la justifica y que

debe combatirse que es la grave situación de desigualdad entonces si lo hacemos en todos los momentos también aquí

y claro que no yo creo también que no es un producto ni fortuito ni casual ni inevitable

tampoco es involuntario tiene causa tiene origen tiene motivo y ahora lo que toca

desde el tiempo que llevamos impulsando la lucha de las mujeres del movimiento

o amparan esos movimientos es combatir esa causa ese origen y ese motivo porque efectivamente

ser las medidas que hoy adoptamos por unanimidad sino que me referiré a que nos queda mucho por hacer y a lo que nos queda por hacer y que no está referido yo creo que al final todas sabemos que lo que se expresa

es la construcción del deporte desde una cultura que no

en su propuesta en una estructura social económica que fundamenta la superioridad del hombre sobre la mujer

más modernamente a partir del siglo diecinueve con la contribución además

lo juegos olímpicos en la época moderna y así ha sido de hecho incluso a principios del siglo veinte

decían que volviéramos al espíritu original antiguo claro a repartir

siempre volvemos a grecia y a lo civilizado pero para retroceder en los derechos de la mujer entonces es una cuestión bastante complicada que

me parece muy acertado con lo que se ha planteado sobre todo porque

cuando se trata de medidas que están orientadas desde las peticiones como he dicho antes de esos movimientos de lucha en favor de la igualdad de mujeres y feministas

más importante nos quedan dos campos por hacer uno es el educativo hay que educar en el deporte en igualdad yo creo que antes han estado comentando lo del nuevo pacto educativo la ley de igualdad en el país vasco

en cuanta porque está construido de manera desigual

una educación en el deporte que sigue perpetuando los estereotipos machistas y creo desde el ámbito de la educación de cómo desarrollamos ese modelo educativo pero también desde el ámbito del control de que no se produzcan o se permitan

participar a parte de la ley de igualdad y el exigir su cumplimiento está la nueva ley que está en el calendario legislativo

estudiar cuáles son los aspectos que se desarrollan de violencia contra las mujeres insisto llevándolo al campo de su origen o causa que es la desigualdad

y en la que también podemos utilizarla trayéndola a este parlamento para ayudar y ser un operador necesario en ese pacto educativo

esos valores de igualdad y no perpetúe aquellos que todavía tenemos una presencia superior y de superioridad de los hombres

con las mujeres en todo el deporte es que lo demás lo habéis dicho todas y el señor barrio

en una gran causa que los liderazgos femeninos son necesarios también en el deporte que eso lo sabemos y comparto las alusiones que hacía

y que solo que a ver si tenemos la misma unanimidad cuando tratemos la educación en igualdad en el pacto educativo y un deporte en igualdad
en la nueva ley del deporte que espero que la traigamos pronto muchas gracias eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak

izan zuelako baina gure animo guztia dute tenemos más obstáculos y menos oportunidades para participar en campeonatos y competir profesionalmente

la participación de las mujeres en el deporte tanto profesional como de base e incluso escolar es minoritario además recibe menor atención

como se ha mencionado aquí pero no solo eso generalmente el lenguaje que se emplea para hablar del deporte practicado entre hombres y mujeres no es el mismo aunque la situación va mejorando y cada vez en euskadi

pocas pueden vivir exclusivamente del deporte tienen que compaginarlo con otros trabajos y muchas al igual que en otras profesiones

tenemos menos arbitras menos entrenadoras menos técnicas

vamos rompiendo techos pero todavía tenemos camino por andar como

en el mundo deportivo menos espacios y menos tiempo en las informaciones es evidente que todos y todas debemos crear conciencia

igualdad de género en el deporte y por supuesto en todos los ámbitos de la vida pero también necesitamos el apoyo la comprensión y la participación de los medios de comunicación

la radio todos ejercen un papel muy importante

y la visibilización del deporte femenino pero un simple análisis de lo que ocupa el deporte femenino en el conjunto de las informaciones periodísticas nos daremos cuenta de que menos espacios minutos y hojas en el periódico

pocos titulares normalmente además noticias de cierre y en ocasiones utilizando palabras que por sí ya son discriminatorias la prensa deportiva suele transmitir una imagen estereotipada de los y las deportistas y emplean un lenguaje sexista

destacan sus aptitudes deportivas de las mujeres frecuentemente su aspecto su vida personal ponen en énfasis en cuestiones que nada tienen que ver con sus capacidades atléticas la poca visibilidad sumada a la utilización de los estereotipos sociales sobre mujeres y hombres

pero no solo los medios hacen esta distinción también la sociedad los eventos masculinos reciben mayor número de espectadores que los femeninos desgraciadamente algunos clubes y federaciones deportivas todavía utilizan el cuerpo de la mujer como reclamo sexual y no deportivo para promocionar sus eventos una imagen muy ilustrativa que todos tenemos en la cabeza por repetitiva es la de las azafatas expuestas en pódiums para ser vistas y recibir a los campeones

actitudes que no aportan nada al evento y que sin embargo perjudican gravemente la imagen de las mujeres cosificándolas pero afortunadamente

ha logrado que por ejemplo la última itzulia la vuelta a euskal herria se suprima esta figura dando así paso a la igualdad en este sentido como se ha comentado aquí ayuntamientos como los de bilbao vitoria zarautz o eibar han aprobado por unanimidad prescindir de esta presencia

especialmente en las vueltas ciclistas por qué porque entienden que las mujeres son tratadas como meros objetos sexuales suelen ser guapas jóvenes con cuerpos esculturales una imagen que entendemos se aleja de los avances del empoderamiento de la mujer en nuestra sociedad avances que todavía deben de superar muchas barreras

y conseguir la igualdad quiero recordar que la primera ley de igualdad se aprobó en nuestro país en euskadi el dos mil cinco abanderada y liderada por el partido nacionalista vasco

zer egiten dut nik berdintasuna benetan eman dadin la igualdad está en todos y todas está en no hacer chistes sexistas

que cosifiquen a la mujer y está en no perpetuar este tipo de roles ni

el partido nacionalista vasco siempre ha estado y estará a favor de las políticas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres la igualdad de las personas

que supuso un hito al permitir avanzar y normalizar las políticas de igualdad en euskadi

es un referente que ha permitido incrementar la presencia de mujeres en los ámbitos de decisión política

es el número de mujeres que formamos parte de esta cámara una representación equilibrada también que se da en las juntas generales gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos

y ha abierto un camino que protege a las mujeres y que se va consolidando día a día volviendo al terreno deportivo quiero traer las palabras que el pasado veintisiete de enero el consejero de cultura de euskadi y deporte el señor zupiria pronunció en comisión

y que la presencia de las deportistas femeninas en su nivel también es alto pero que hay retos y el suyo pasa por lograr en esta legislatura una verdadera igualdad

asociaciones ciudadanos y entidades para trabajar en este ámbito

por unanimidad supone un paso adelante en este objetivo y estamos satisfechos porque mejora la proposición inicial al recoger la participación también de agentes privados

llegado porque resulta fundamental que en esta materia rememos en la misma dirección porque nos involucra y nos importa a todas y a todos eskerrik asko eskerrik asko molina

gracias señora presidenta nuestro grupo trae para finalizar este pleno

aquí una proposición no de ley que desde luego suele ser habitual en nuestro grupo y que seguiremos presentándola y presentándola

no sé si conseguiré darle un enfoque más original que otras veces pero lo voy a intentar a ver si conseguimos que todos reflexionemos vamos a enfocar la defensa de esta proposición no de ley haciendo que pivote sobre dos

el primero es la injusticia que se está produciendo en estos momentos y el segundo los prejuicios a qué me refiero cuando digo que la situación actual es fundamentalmente injusta pues me refiero a lo siguiente

aquí estamos hablando muchas veces de no quieren hablar algunos de escuela vasca

pública vasca o hablamos de escuela concertada y manifestamos hablamos siempre de la escuela

eskerrik asko pero es que de lo que de verdad hemos venido a hablar aquí es de derechos fundamentales de las personas

y los sistemas educativos son constructos con constructos quiero decir que son acuerdos artificiales

y que pueden ser cambiados en cualquier momento pero qué es lo que tenemos realmente aquí aquí tenemos una serie de personas

que tienen una serie de niños y niñas y que tienen el derecho a la educación

verdaderamente estamos hablando de ahí en adelante lo demás son constructos

en unas obligaciones y qué obligaciones les imponemos a todas estas personas y a todas estas familias pues que paguen impuestos para

si todos pagamos los mismos impuestos

por qué unos ese derecho lo reciben al cien por ciento y otros lo reciben solo al setenta por ciento porque todos tienen derecho a la educación y todos están pagando los mismos impuestos y de elegir qué modelo quiere uno de enseñanza es otro derecho otro derecho que también

entonces a esa injusticia me refería yo personas con los mismos derechos

con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que están pagando los mismos impuestos solo reciben unos ese derecho al setenta por ciento y otros lo reciben al cien por ciento aquí hay una injusticia real alguien me podrá decir bueno pero con esos impuestos en la escuela pública se ofrece plaza para todos

eso no es verdad el cincuenta por ciento prácticamente de nuestras familias quieren ejercer su derecho a la educación en una red concertada y tienen ese derecho porque la libertad de elección está garantizada pero por hacer eso

se les penaliza y uno diría bueno pero vale es que se les penaliza pero lo que tienen que aportar a los centros luego es deducible

de enmendar la justicia pero no no le cobran exactamente los mismos impuestos y le devuelven el setenta por ciento del servicio y a otros le devuelven el cien por ciento desde luego la red pública no podría ni en sueños

ni física ni económicamente ofrecer una plaza a todos los niños eso sin contar que sería forzar

entonces mire es que nuestro grupo tiene esta cosa de que hay que ayudar a los que están sufriendo injusticias siempre nos han marcado así

pero cuando hay alguien que está siendo discriminado y que está sufriendo una injusticia creemos que es nuestro deber dar la cara por ellos

nosotros estamos viendo esta situación como una injusticia repito el argumento cien por ciento de pago de impuestos y unos

bueno pero a ver uno puede elegir la concertada por muchos motivos uno porque quiere estar en una red que siempre tradicionalmente ha dado mucha importancia al euskera y entonces va a una ikastola concertada otros puede ser porque entienden que los movimientos cooperativos son muy importantes y va

otros pueden entender que los valores del humanismo cristiano no me estoy refiriendo a la religión

son fundamentales y elige una escuela que defienda

otro puede ser que esté más cerca de su casa o que sea el colegio al que han ido los padres hay mil razones pero lo que sigue siendo

es que esa elección les cuesta una injusticia les cuesta que solo reciban el setenta por ciento del valor entonces yo les he dicho nosotros intentamos que si es posible

sobre esto y con ese primer concepto el concepto de la injusticia que se está dando y luego vamos al segundo concepto los prejuicios ideológicos a ver

que los ricos debieran pagarse su propia sanidad venía de no me acuerdo quién lo ha dicho que los ricos tendrían que pagarse su propia sanidad

ya les digo me ha retrotraído al siglo veinte eso sin contar que con el sueldo que tenemos aquí nosotros somos ricos o sea que aquí nadie vaya osakidetza porque nosotros tenemos unos sueldos que no son normales

todos a la privada y ya no digo nada si es un matrimonio que está ingresando

en muchos sitios se acabó osakidetza para nosotros no es pero volviendo a esos conceptos del siglo veinte en este tema hay tantos prejuicios

tan falsa porque miren yo les miro a todos ustedes y veo

en cierto espectro en otros veo menos pero vamos si es que aquí hiciéramos es que yo había estado mirando los estos y créanme tengo razón entonces

un examen de cuántas personas aquí

a un colegio concertado y cuántos a un colegio público por lo menos saldría fifty fifty

entonces no seamos falsos por favor seamos justos

si uno paga todos los impuestos tendrá derecho a recibir el servicio completo y segundo quitemos esos conceptos del siglo veinte de los ricos los explotadores también de otro oído

seres horribles retorcidos espantosos

que llevan a sus hijos a la concertada pues no señores aquí hablamos mucho de aniztasuna hablamos mucho de que

y luego aunque no sea más que por

cuando dedicamos esos adjetivos calificativos tan maravillosos a la escuela pública por omisión estamos diciendo

yo espero que ustedes reflexionen no lo

es quedarse solo defendiendo a la sociedad contra una injusticia es un honor y nos ha costado mucho pero es un honor del que hemos gustado bastantes veces

les pido que reflexionen sobre estos dos conceptos no tiene que haber prejuicios centros concertados hay de todos incluso hay centros

me parece que era de eh bildu a los más pobres de entre los más pobres y en una terminología más moderna a los más excluidos de los más excluidos hay centros concertados que se dedican a eso y no ni uno ni dos ni tres

hay un montón y le voy a decir una cosa que yo no sé en qué país vivirán ustedes pero yo conozco colegios públicos

que se sienten bastante elitistas

con otro colegio público de sitios más populares se defienden como gatos tripa arriba y estoy segura que no me va a dar la razón pero que la consejera ha tenido esa experiencia porque es que yo la he tenido en mi entorno muy cercano un colegio público

tuvo que unirse a un colegio público que era de una zona mucho más deprimida y aquello fue

pero lo que digo es que no hay que tener prejuicios por favor seamos justos igual de obligaciones es decir igual de pago de impuestos

es decir recibir el cien por ciento del servicio y por favor

en los públicos y en los concertados es más puedo darles algunos públicos que también cobran cuotas créanme los hay los hay

a un colegio concertado y reconozcamos aunque sea por un poco de autoestima que ni somos tan horribles ni tan

ni tan nada de nada igualdad de derechos igualdad de obligaciones muchas gracias

berma dezake por lo que debe ser la única financiada con fondos públicos

gracias presidenta mire sin prejuicios previos señora bengoechea pero desde presupuestos distintos a los que usted establecía en esta tribuna evidentemente y me va a permitir que haga una pequeña descripción

en esta situación en toda españa y aquí también en euskadi

se ha venido instaurando en españa centros escolares privados los centros privados concertados nacieron con la democracia cuando se expande el sistema público pero en su nacimiento evidentemente los centros públicos eran absolutamente insuficientes

sin embargo esto fue cambiando paulatinamente por la gran demanda de centros escolares que había y la dificultad de cubrir la totalidad de la demanda de centros públicos

el que con la aprobación de la ley orgánica del derecho a la educación estableció el criterio

con centros privados siempre y cuando cumpliesen una función social y que funcionasen bajo criterios de

y no segregación en la admisión del alumnado criterios que a día de hoy en el dos mil diecisiete siguen siendo exactamente igual de vigentes que lo eran entonces

por desgracia que no siempre se cumplen como debiera ni la función social ni la gratuidad

que no se puede generalizar porque no sería justo pero existen todavía datos todos conocemos casos concretos en un territorio y en otro fuera de españa

el criterio de gratuidad y el criterio de no segregación porque se cobran bajo camuflajes de uno y otro tipo cuotas distintas que hacen que ese centro no sea gratuito teniendo en cuenta además

que los profesores de la red concertada cobran directamente de la administración

que puede tener cualquier centro educativo por lo tanto el resto de costes son añadidos a lo esencial lo que constituye la parte más grande económicamente

político espero que no le oiga a usted hablar como decían ustedes no hace mucho del famoso cheque escolar que venía a ser querer tratar de forma igual a quien es desigual y eso es absolutamente injusto hay que tratar de forma desigual a quien es desigual

no se puede tratar igual más que a los iguales si no son iguales y no lo son por desgracia hay mucha gente en españa con muchas diferencias económicas no se les puede tratar exactamente igual

las desigualdades bien en cualquier caso con esa evolución

como complemento a la red pública como complemento no como sustitutos de la red pública y siempre de forma subsidiaria de la red

y ahora mismo no sé estamos en una situación en la que la mayor parte de los centros privados se han hecho concertados salvo raras excepciones los que de verdad son colegios de élite y se acogen al concierto educativo hay que reconocer también que la escuela pública a lo largo de este tiempo ha ido mejorando cuantitativa y cualitativamente y nosotros siempre hemos defendido que eso tiene que seguir avanzando en ese sentido

en su mejora para que sea de verdad el eje del sistema educativo vasco que como decía la señora zabala hay veces que no parece que esté que la escuela pública sea el eje del sistema educativo vasco aunque siga siendo en esta especie de equilibrio que tenemos en euskadi entre la red privada y la red

pública que la concertada pero en todo caso en fin tenemos una situación que no tiene parangón desde luego en el resto de españa ni tampoco en la mayor parte de los países de europa

que tienen todos los niños y niñas garantizando intentándolo al menos una oferta pública suficiente en todos los niveles y modalidades

una situación muy específica y muy concreta que era que teníamos no dos redes educativas aquí teníamos tres la privada las ikastolas y la red pública y por eso hubo que hacer un esfuerzo especial primero para intentar que confluyesen la red pública en la red de ikastolas una buena parte de los cuales así lo hizo

de supervivencia de la escuela pública frente a la concertada que inicialmente más potente y ese es el modelo que tenemos aquí en euskadi que ha funcionado razonablemente bien pero que nosotros al menos los socialistas pensamos que tiene que ir variando

escuela pública y por lo tanto la administración pública en españa y aquí también tendrá que hacer un esfuerzo paulatino de nuevos equipamientos públicos de nuevos colegios públicos que den lugar a que se cubra por la red pública la mayor parte de la demanda existente

de los centros públicos no es distinto es sustancialmente del de los centros concertados es igual o incluso mejor

en centros públicos y en centros concertados siempre que se parta de igualdad de

la comparación nuestro objetivo como hablábamos en el punto anterior es conseguir ese gran pacto educativo que culmine con una nueva ley vasca de educación en el que se reconozca como lo está ahora el papel esencial de la escuela pública que garantiza la igualdad de oportunidades

entendiendo la realidad del sistema educativo vasco que tiene elementos diferenciales y por supuesto el derecho que las familias tienen de matricular a sus hijos e hijas en un determinado centro escolar lo que no podemos permitir es que exista ninguna brecha entre redes ni entre centros educativos de la misma comunidad al final lo que venimos a discutir aquí lo que hoy plantea usted

y es por eso que nuestra enmienda instamos al gobierno vasco a que establezca las bases reguladoras para la financiación del conjunto del sistema educativo y que siga profundizando en la adecuación

no sé si eso conlleva más aportación económica o no o conlleva más control del dinero que llega a los centros concertados por parte de la administración pública

y de la exigencia de control también de las cuotas que a veces no se cobran de la forma que debieran hacerse si es que lo debieran hacer los centros privados que existen en la comunidad creo que lo que se plantea es algo muy razonable y que podría ser perfectamente asumible por ustedes ya sé que ustedes

de identificación política respecto a cómo ven ustedes la educación

pero también quiero decirle que lo que nosotros defendemos en la enmienda que presentamos conjuntamente con el partido nacionalista vasco recoge más que suficientemente ese criterio de rigor

de la red concertada y hay una cautela que usted no ha nombrado aquí pero que siempre debe estar en la administración pública y por lo menos

no se puede confundir el derecho a elegir libremente el centro educativo

con usar esos fondos para obtener beneficios no del todo lícitos en algunos centros

sino a garantizar la educación de los niños en igualdad de condiciones y hay casos le reconozco que afortunadamente no son la mayoría

o en los beneficios del centro en cuestión que lo ha solicitado y por eso hay que ser exigente

a la hora de controlar el flujo financiero que va a ese tipo de centros eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

creemos que a la hora de definir nuestro sistema educativo y coincidimos con las palabras de la consejera en este sentido es fundamental la búsqueda de un pacto educativo que culmine en una ley vasca de educación en la cual se reconozca el papel esencial de la escuela pública además de que también pues se establezcan entre otras muchas cosas las bases regulatorias para la financiación

un pacto además que debe partir de la reflexión conjunta de todos los agentes educativos sociales y políticos con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuestro sistema educativo debemos entre todas y todos estructurar y reforzar la estabilidad

profundizando en una educación inclusiva y equitativa que avance hacia la excelencia debemos consolidar un sistema educativo que se caracterice por su estabilidad por el acuerdo y por el consenso

educación acordada e integradora que dé respuesta a las nuevas demandas y necesidades educativas

bases sobre las que creemos que es posible construir un acuerdo en este sentido son la voluntad el diálogo la participación la generosidad

la visión del sistema educativo en su conjunto y también cómo no la visión de país hezkuntza epe luzerako pentsatu behar da aldaketak luzaroan iraun dezaten egin behar dira

entendemos que la ley vasca de educación es un instrumento no un objetivo en sí helburua abiapuntu akordio bat lortzea izango litzateke oinarrizko akordio bat

desde el punto de vista integral de la educación dirigida a nuestra sociedad actual consideramos que el sistema educativo vasco tiene que seguir dando pasos en su calidad hacia la excelencia a través de conceptos como la convivencia la pluralidad la libertad de pensamiento la defensa a la diversidad la paz la igualdad de oportunidades y la tolerancia

educativo inclusivo que se vería plasmado entre otras muchas cosas en una nueva ley vasca de educación una ley acordada insisto consensuada integradora

necesidades como por ejemplo la financiación de los centros educativos

concertada de acuerdo con las mejoras introducidas en los últimos años en la red pública

una ley del sistema educativo vasco en ese entre tiempo resulta inaplazable ir dando pasos hacia una adecuación de los conciertos educativos profundizando en el compromiso educativo y social a la vez que consecuentemente en el incremento de la financiación

begira bengoechea

señora ubera no sabe para mí lo serio que es esto

ahora vamos a ver la seriedad se expresa en que no digo que usted lo haga pero

y sobrevolar por arriba o la seriedad es de verdad hincarle el diente y poner ejemplos reales

a igualdad de derechos igualdad de obligaciones totalmente de acuerdo y si hay alguna desviación que seguro que lo hay porque el ser humano es como es

a la consejería de que lo controle también lo ha dicho el señor pastor no puedo estar más de acuerdo claro que sí a igualdad de derechos igualdad de obligaciones eso es seguro

yo de verdad lo siento pero en su intervención he visto retratado precisamente aquello que yo hablaba de los prejuicios de los prejuicios

son los que van a la escuela pública y tal me ha dejado con una gran curiosidad tengo que ir a zarautz y tengo que visitar los colegios de verdad porque es que

lo que aparte de los conocimientos que tengamos lo que nos da el pulso de la gente es haber ido a los sitios y haberlos visto

conozco muchas partes de gipuzkoa se lo aseguro porque he viajado mucho por gipuzkoa pero quizá irun no sea un buen ejemplo

va clase media normal y corriente y qué y eso es una cosa que le podemos pedir a la consejería

que lo vigile bien las personas inmigrantes se reparten bastante por todos los centros

por el modelo lingüístico nosotros no tenemos modelo

pero tenemos modelos b vergonzantes que en realidad uno solo

y sí es cierto que ahí hay una concentración mayor pero es por un problema lingüístico el único

a ver si verdaderamente los colegios públicos van solo los inmigrantes y las personas de ingresos más bajos porque entonces irun es muy rara en irun al colegio público va la gente de clase media

es la carne cómo son las cosas podíamos empezar aquí a hacer grandes discursos con palabras larguísimas bueno y si los hacemos en euskera con esas palabras nuevas inventadas que tienen seis o siete

pero yo le digo mis hijos mis hijos mi

clase media pura y dura afortunadamente trabajando los dos van a llevar a su hija

es que me está usted asustando o sea de verdad en serio su intervención ha sido

prejuicio duro y duro señor pastor hay una cosa que ha dicho la señora ubera que tiene toda la razón el problema no es tanto de

pero en gipuzkoa cuando usted habla de colegios privados en gipuzkoa no hay ninguno o

en gipuzkoa no hay ni un solo colegio privado son todos o concertados o públicos zer esan du hori

bueno para terminar entonces por favor se lo repito cuidado con los prejuicios

derechos igualdad de obligaciones estamos de acuerdo con eso y otra cosa con la que estoy de acuerdo con la señora ubera es que la ley no es no va a ser la panacea de todos

que hagan que hagan las leyes a mí que me dejen hacer los reglamentos eso ha sido

que se ha oído mucho la ley no va a ser la panacea de todo lo que va a ser

soltando nudos poco a poco señora ubera es el prescindir todo lo que podamos de nuestros prejuicios

no tener manía a la mitad de las familias vascas porque hay veces que yo aquí detecto que hay

que tienen manía a la mitad de la ciudadanía vasca a la mitad de las familias vascas que eligen la concertada por favor no les tengamos manía

y como decía antes a igualdad de derechos igualdad de obligaciones y viceversa muchas gracias eskerrik asko

si no tiene inconveniente bueno he oído alguna expresión tremendamente pintoresca por parte de la señora zabala

quería centrarme en el aspecto en el que estamos yo sinceramente sin ningún prejuicio previo señora bengoechea créame creo que la enmienda que presentamos es una enmienda muy razonable muy equilibrada que hablo de dos asuntos y se habla de dos asuntos que todo el mundo tendría que coincidir en que son importantes apoyar una la necesidad de un pacto educativo y otra el que se adecúen

con el rigor necesario y mediante la inspección y la evaluación del destino de esos fondos no creo que haya nada que no pueda ser aprovechable en ninguno de los dos puntos

y por mantener el prurito en fin puede usted votar perfectamente esta enmienda de transacción que hemos presentado el grupo nacionalista y el grupo socialista

bai arratsalde on berriro bueno en este segundo turno sí que me gustaría reiterar que la educación para cualquier gobierno es un tema central en su agenda y cómo no para cualquier sociedad

cualquier intervención en este sentido sea para hablar de financiación o de cualquier otro ámbito de la educación implica el máximo consenso y

presentes en esta cámara nosotros creemos que este acuerdo que posteriormente se plasmaría en una ley vasca de educación

se ha puesto sobre la mesa el tema de la financiación de los centros concertados

birpasatuz eta lege berri baten bidez hori guztia egiteko coincido con la señora ubera en que la ley no es la panacea o sea no va a dar solución a todos los problemas pero sí que en la discusión y en el debate sobre esa ley se pueden poner sobre la mesa un montón

respuesta y tendrán cabida y serán plasmadas en la propia ley por lo tanto

coincido con el señor pastor en que es una enmienda que se puede aceptar por la gran mayoría de grupos de esta cámara e invitar a todos ellos a que se sumen a ella